nadie me dijo que mes a mes me estaban pagando lo que no me correspondía y ahora me reclaman un dinero y desconozco el motivo a mí me pone que cobré más de tres mil euros de manera indebida y que

cómo si carezco de ingresos más allá que la rgi edo

ez zitzaiona ordaindu egin diote edozein kasutan el pago indebido no es fraude creo que lo tenemos que decir alto y claro creo que se lo debemos a las miles de personas que de una manera u otra se les ha puesto bajo sospecha

fundamentalmente de una mala gestión de la administración y de una forma de hacer las cosas absolutamente nefasta administrazioak

apurretik instamos al gobierno a que respete y cumpla en las comunicaciones con las personas preceptoras de la renta de garantía de ingresos los procedimientos y garantías jurídicas necesarias entre ellas las manifestadas por el ararteko asegurando un tratamiento digno

para ello las resoluciones deben de ser individuales y motivadas y por último le instamos a que ponga fin a esta situación fijando

a gestionar en el plazo de dos meses las modificaciones que se den en las personas preceptoras de la renta de garantía de ingresos informando de ello a cada persona cuantías conceptos meses abriendo un plazo de alegaciones y remitiendo finalmente

es evidente que para ello lanbide debe tener los suficientes recursos técnicos y personas que hoy en día no los tiene hau da

de las cartas remitidas a los perceptores de ayudas sociales para recuperar las cantidades adeudadas es un claro ejemplo de la mala gestión de este gobierno

ante un caso claramente ilustrativo como decía de esta mala gestión de este gobierno en lanbide servicio vasco de empleo un servicio esencial

atribuidos el objeto del envío de estas cartas encuadrado

era recuperar la cantidad abultada de cobros indebidos pagos indebidos depende dónde pongamos

sucesivas comparecencias en esta cámara el consejero ha puesto en sus declaraciones el énfasis en las dos partes ha reconocido

en la propia gestión de lanbide y en la propia administración en consecuencia

situaciones de fraude por parte de los perceptores que no comunican los requisitos o el cambio de los requisitos o de sus circunstancias en un momento determinado

esas ayudas económicas previstas en la ley aún cuanto saben que no los requisitos señalaba la cantidad abultada de estas cantidades efectivamente hace unos meses conocíamos que la cantidad correspondiente a la gestión en lanbide de cobros indebidos o pagos indebidos

de los cuales todavía estaban sin recuperar cincuenta y seis coma tres millónes de euros hace unas semanas esa cifra se nos decía que ascendía a más de setenta millónes de euros y ayer mismo conocimos respuesta a una pregunta parlamentaria que esa cantidad

dos mil doce y dos mil trece ascendía a sesenta y tres millónes de euros si bien a día de hoy la cantidad total y contemplando las diversas situaciones en las que se encuentran los perceptores

millónes de euros creemos que es una cantidad abultada y que pone de manifiesto como señalada la mala gestión de lanbide en esta cuestión

para informar a los perceptores de la rgi de las cantidades

remesa se han enviado posteriormente otro montante de cartas

adeudan cantidades con la administración queremos decir claramente desde el grupo popular que este gobierno se ha visto claramente obligado por las circunstancias

y forzado por la opinión pública a poner en marcha esta campaña porque sinceramente creemos que si estos datos no se hubieran echo públicos

la ineficiencia del funcionamiento de lanbide responsabilidad de este gobierno este gobierno se hubiera quedado de brazos cruzados y por lo tanto se vio a lanzar una campaña que como también se ha dicho aquí

y un caos en el funcionamiento de lanbide berriro ere

de este gobierno en la gestión de lanbide ahí esta la cifra de pagos indebidos

cantidades adeudadas es una cantidad pública respondida a una pregunta formulada o a varias preguntas mejor dicho formuladas por este grupo

y ahí está que se han articulado procedimientos que están resultando absolutamente inadecuados para recuperar esas cantidades aparte delas

que el episodio de las cartas remitidas de las misivas remitidas ha ocasionado en los perceptores de ayudas sociales nos decía hace

me imagino que a día de hoy sí es cierto que será mayor pero que sería conveniente saber dos cuestiones en relación a esta campaña

una pregunta al respecto a este gobierno que todavía no está contestada pero sí sería conveniente saber cuánto ha costado a los ciudadanos y cuánto nos ha costado a los ciudadanos poner esta campaña en marcha de dudosos resultados y que como decía ha generado una frustración a las personas a las que se ha

nos cueste más las cintas que el manto agerian berriro geratu da gobernu honen

porrota de nuevo por tanto se constata con la puesta en marcha de esta campaña el fracaso de este gobierno en la gestión

numerosos aspectos relacionados con la gestión de las ayudas sociales no están funcionando adecuadamente señor consejero en el plan de trabajo del año dos mil trece

el asegurar el acceso a las prestaciones y el cumplimiento de los plazos de resolución se han agilizado los plazos no vamos a reconocer lo contrario de resolución de los expedientes que era una cuestión pendiente pero a tenor claramente de los resultados que estamos conociendo

está claro que esos expedientes no se han resuelto de forma adecuada o que podríamos concluir incluso que se están resolviendo muchos de ellos de forma absolutamente inadecuada por otra parte señor consejero no se están desarrollando los instrumentos necesarios para el funcionamiento de lanbide de acuerdo a los fines y objetivos

que cumplir lanbide servicio vasco de empleo se están retrasando cuestiones inaplazables como es la aprobación de una rpt

sobre esta cuestión y aprovechó más bien para hablar de otras cuestiones

hablar de la relación de puestos de trabajo que como usted bien decía era una cuestión urgente era una necesidad

y que es algo que proporciona legitimidad a lanbide a qué está esperando este gobierno para aprobar de una vez por todas la relación de puestos de trabajo de lanbide la reorganización de lanbide esa reorganización que es absolutamente necesaria para poner en marcha el plan estratégico de lanbide

y que queda en papel mojado porque no se pueden poner en marcha todas las previsiones que se contienen en este plan estratégico

las deficiencias del funcionamiento de lanbide porque como decía el servicio vasco de empleo es un servicio esencial y tiene unos fines y objetivos muy claros en un momento en que

en un momento en que esas personas más que nunca tienen que tener una oportunidad de salir del sistema de protección porque el sistema de protección

y esa oportunidad que nos daba la transferencia de las políticas activas de empleo y de lanbide de gestionar estas prestaciones veo que se está quedando en nada señor consejero por la inacción absoluta de este gobierno en relación al cumplimiento de los fines y habilitar los instrumentos

para que lanbide cumpla sus objetivos como es la aprobación de una rpt y por otra parte y voy finalizando desde luego consideramos absolutamente inoportuno inadecuadas determinadas

que pretenden suplir la mala gestión pidiendo un esfuerzo adicional a los ciudadanos no se puede señor consejero plantear subir los impuestos o crear una nueva figura impositiva cuando uno como responsable político tiene que hacer esfuerzos

de las cosas que no funcionan bien y que no funcionan adecuadamente como es el caso de lanbide este gobierno por tanto no puede convertir a los ciudadanos en páganos de su mala gestión y señor consejero yo le aconsejaría que haga una revisión de la mala gestión de los servicios públicos en este caso de lo que es lanbide

y corrija las deficiencias que a la vista están de este servicio público esencial nosotros vamos a mantener

que va en otra línea a las cuestiones que nosotros planteábamos y que son absolutamente necesarias en este momento eran las cuestiones muchas de ellas que planteamos en el debate de la pasada semana y que algunos de ustedes

y como somos coherentes pedimos lo mismo y pedimos medidas necesarias

acabo señora presidenta pedimos también la redefinición de la estructura organizativa de lanbide con la aprobación de la rpt y pedimos también que se constituya una unidad de control interno con un servicio de inspección específico destinado al control y seguimiento de las prestaciones económicas previstas en la legislación vigente como siempre lo hemos hecho lo hicimos la semana pasada lo hemos hecho esta semana lo hemos hecho anteriormente y lo seguiremos haciendo si este gobierno

lehendakari consejero señorías lo cierto es que el pasado veintidós de septiembre diez mil personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos y de la prestación complementaria de vivienda recibían en sus domicilios una comunicación masiva

de forma indebida y les instaba a un pago voluntario antes del inicio de la instrucción del procedimiento de reintegro lanbide en esa carta

en el reintegro indicado la posibilidad de cancelación de esas cantidades bien por una devolución única de la totalidad de la deuda antes del treinta y uno de octubre otra opción era pago fraccionado para cantidades superiores a ciento ochenta y cuatro coma ochenta y cuatro euros aceptando descontar dichas cantidades mes a mes de sus cuentas bancarias hasta el reintegro total del importe cobrado

y en el caso de las personas que percibían la renta de garantía de ingresos de lanbide por su propia cuenta lanbide establecía la cantidad a reintegrar un treinta por ciento de la cuantía de su rgi mensual hasta que la deuda fuera satisfecha en su totalidad

lanbide les comunicará el importe de la deuda que les quedaría pendiente de pago pudiendo solicitar su fraccionamiento lanbide

hasta que se iniciará el procedimiento de reintegro ocultaban información necesaria para una defensa efectiva y con garantías a las personas a las que se les estaba enviando dicha carta es de destacar así mismo que en la comunicación la administración ofrecía como único cauce de consulta dos números de teléfono dos únicos

que quedaron totalmente colapsados y generaron una gran incertidumbre a estas personas afectadas

en defender la eficacia en la gestión de los recursos públicos y eso significa también velar por que cada euro llegue al destino para el que se ha previsto ese desembolso pero la carga de la prueba ante deficiencias de la gestión

en la administración es a lanbide a quien corresponde escrutar primero cada uno de los euros pagados y establecer después los mecanismos de comunicación de la administración

que son por definición personas en riesgo de exclusión social la forma de comunicar y la elección del momento cuando se han alentado debates sobre supuestos falsos nos parece un

de que existe un fraude social generalizado cuando en realidad

indebidos sí consejero es cierto es lo que la sociedad está percibiendo es lo que la sociedad está leyendo en los medios de comunicación

está escuchando en los medios de comunicación usted personalmente aparece día sí y día también en esos medios de comunicación haciendo de notario y contando lo que está ocurriendo sin tomar decisiones para resolver los problemas el gobierno vasco lanbide ha iniciado un procedimiento a nuestro entender premeditado

unas cantidades indebidamente pagadas causando alarma entre muchas personas que son perceptoras de la renta de garantías y que apenas cubren sus necesidades básicas

mostrado contrarias a colaborar con lanbide para aclarar a qué se debieron esos pagos indebidos y en qué momento

aplazado de los mismos atendiendo a su situación económica la situación económica que están viviendo cada una de esas personas afectadas

que no se debe trasladar a la sociedad un mensaje falso y cargar toda la responsabilidad a las personas que peor lo están pasando en esta crisis económica que dura ya demasiado

está azotando en este momento de manera importante a nuestra comunidad autónoma vasca conocíamos los datos de los perceptores de la renta de garantías en el mes de octubre y vuelven nuevamente a subir el señor aburto reconoció en el pleno de control del seis de octubre en la pregunta oral que hicimos los socialistas vascos que no pretendían

como defraudadoras que solo pretendían medir su voluntad la voluntad de las mismas para abonar los pagos indebidos a lanbide

lo habían hecho bien y que entendía la alarma social que se había generado

había sido un error que no se volvería a repetir el señor aburto reconocía también que hubo defectos en el sistema de atención telefónica que se indicaba en dicha carta

los socialistas nos quedamos con la voluntad del señor aburto para reconducir esta situación y efectivamente para que no vuelva a ocurrir en un futuro pero ahí se ha quedado en la voluntad nos faltan decisiones señor aburto su gobierno tiene que tomar decisiones y rápido para reconducir esta situación

para recordarles que el sistema de protección social es una inversión imprescindible como lo es la sanidad la educación y las pensiones que revierte en positivo en nuestro producto interior bruto y que debemos defenderlo frente a quienes de manera torticera o interesada

la ley pone medios en nuestras manos para garantizar que los recursos lleguen a quienes los necesitan y mecanismos de control para que nadie se aproveche del sistema y si son los mecanismos los que fallan es la administración las administraciones

reforzar estos instrumentos el grupo parlamentario socialista está dispuesto a apoyar las propuestas que sirvan para reforzar el sistema de protección social en euskadi debatiremos todas las propuestas cuando lleguen a este parlamento como lo estamos haciendo hoy

que van a destruir el sistema y van a incendiar la sociedad hemos llegado a un acuerdo transaccional con eh bildu con los cinco puntos que ha leído

y también se recogen casi todos los planteamientos que de forma muy coherente han hecho las personas afectadas al resto de grupos les pido que lean atentamente el texto por favor léanlo atentamente

la niña del señor aburto esa niña de siete años que tiene un hermano

que no tiene ni ahorros ni trabajo que comen y viven gracias a la renta de garantía de ingresos

euros y se lo ofrece devolver en treinta y dos cómodos plazos a razón de ciento ochenta y ocho coma ochenta y cuatro

hasta el año dos mil dieciséis señorías qué administración tenemos que a una mujer con dos hijos y sin recursos económicos le da la posibilidad

dos mil dieciséis pero no le dice por qué ha contraído esa deuda no resulta un tanto complicada

por nuestra parte volvemos a insistir en que el resto de los grupos lean la enmienda transada y por favor que apoyen con sus votos unos planteamientos que son para resolver los problemas de aquellas personas que han recibido

no sabemos si justificadamente o no unos pagos indebidos

es muy complicada y están en una situación de riesgo de exclusión social por lo tanto les pido que lo lean y que tomen la decisión adecuada con sus votos porque de ellos dependen

y muchas otras más que están en camino por nuestra parte nada más

sí gracias presidenta buenos días a todos hablamos nuevamente

realizados por lanbide durante los últimos años a miles de ciudadanos y sobre todo yo creo de la situación en la que estos ciudadanos quedan

reciben la comunicación de lanbide en la que les informa de la situación en la que se encuentran hablamos y analizamos las razones por las cuales se han realizado estos pagos indebidos y el modo en que ha actuado lanbide y el modo en que podemos reducir al mínimo en el futuro estos pagos e impedir de ese modo perjuicios posteriores a los beneficiarios hablamos de las deficiencias existentes en lanbide que no son nuevas vienen de atrás vienen del gobierno anterior y del modo en que ha actuado el actual gobierno de los errores cometidos y del modo en que deberán actuar los preceptores de cuantías que no les correspondían

que deberán darse para evitar en el futuro situaciones semejantes hablamos también del modo en que estas personas deberán devolver el dinero recibido indebidamente al objeto de que los errores de lanbide no les perjudiquen o les perjudiquen lo menos posible

correspondientes y que todos los procedimientos se produzcan respetando obviamente la legalidad vigente en cualquier caso ha quedado de manifiesto

las enormes deficiencias de lanbide y el hecho de que estas deficiencias por un lado perjudican de un modo u otro a miles de ciudadanos y por otro lado que estas deficiencias son aprovechadas por algunos para insistir en el fraude en el sistema vasco de protección social y finalmente mezclarlo todo y por lo tanto pensamos que hay que actuar en dos frentes al menos por un lado hacer todo lo posible para mejorar el funcionamiento de lanbide que corresponde básicamente al gobierno y por otro lado y esto nos corresponde a todos deslegitimar

a quienes pretenden vendernos la idea de que todo lo que ocurre en lanbide es fraude y que el fraude es generalizado lo cierto es que lanbide ha sido un verdadero desastre desde que los socialistas decidieron asumir la tramitación

y la prestación complementaria de vivienda desde el propio gobierno vasco se produjo

reconocido creo que por todos y también es cierto que se han producido algunas leves mejoras en los últimos tiempos pero que va todo demasiado lento

ese cometido la consecuencia es que las personas más vulnerables de la sociedad es decir los perceptores de las ayudas sociales son quienes están sufriendo esta situación

sus funciones también el objetivo de la empleabilidad y para ello se tomen determinadas medidas para alcanzar esos objetivos que todos deberíamos compartir nosotros hemos presentado una que pensamos mejoraba considerablemente el texto original y que creo que resume lo que el gobierno debería hacer para resolver esta situación

critique el deficiente funcionamiento de lanbide que ha llevado a que miles de perceptores de ayudas sociales se vean obligados a tener que devolver cantidades de dinero pagadas de forma incorrecta por este organismo pedimos exigir a lanbide que en sus comunicaciones con los perceptores de la renta de garantía de ingresos siga todos los procedimientos legales

a la hora de informarles de sus derechos sin crear alarmas innecesarias como ha ocurrido exigir a lanbide

que va a tener para las personas que han sufrido los pagos indebidos realizados por lanbide a la hora de devolverlos y exigir al gobierno que refuerce la estructura

y materiales necesarios para que no vuelvan a producirse los errores masivos que se han estando registrando

reciente lo cierto es que hay demasiadas cosas que se han hecho demasiado mal demasiados errores que no se terminan de corregir los propios pagos indebidos

de lanbide las cartas y el modo en que se enviaron las cartas y el contenido de las cartas que se enviaron de forma masiva además lo que provocó el colapso de las propias oficinas y de las centralitas telefónicas el hecho de que las cartas enviadas no pueden considerarse un requerimiento formal de devolución porque ni se hizo por carta certificada

que soportara y justificara la supuesta infracción

o no se decía ni a qué meses corresponde el pago indebido ni si hay opciones de hacer alegaciones o recursos es decir un cúmulo de errores que debemos resolver cuanto antes nosotros le interpelábamos al consejero sobre la cuestión el

porque los programas informáticos no son perfectos porque los procedimientos no pueden prever todas y cada una de las situaciones diferentes y cambiantes de familias y personas

todo esto desde el propio consejero hasta el último trabajador o trabajadora de lanbide somos infalibles

el propio consejero reconocía una serie de errores pedía disculpas públicas y decía que el gobierno no ha acertado con la atención telefónica tal vez decía podríamos haber evitado las aglomeraciones registradas en algunas oficinas y de forma puntual y en la central telefónica habiendo

en varias fases y no todas a la vez en fin yo creo que lo que hay que hacer ahora es pasar de las palabras a los hechos se han reconocido los errores

todas las medidas que sean necesarias para corregir estos errores la duda que tenemos es si este gobierno y este consejero

y en concreto durante los primeros dos años de legislatura en relación a esta cuestión van a ser capaces de dar la vuelta a la situación

funcione correctamente esa es la duda que nosotros tenemos a partir de ahora en todo caso nosotros se lo exigimos exigimos al gobierno que ponga en marcha

ofrecemos y cada uno con sus enmiendas pone en el debate creo que todas ellas o la mayoría de ellas son propuestas perfectamente razonables y

será que el gobierno las atienda para que lanbide pueda funcionar cuanto antes en fin nosotros votaremos nuestra enmienda

con ningún otro grupo pensamos que aquí se recoge lo fundamental de la cuestión gracias eskerrik asko maneiro jauna

bertan edukiko dituzte legeak arautzen dituen berme guztiak reiteramos es una comunicación previa que precisamente

es notificar la existencia de la cantidad indebidamente recibida y en el supuesto de que el o la perceptora estuviera de acuerdo con la misma pudiera abonarla

o de forma fraccionada se hizo de esta forma por ayudar

para que no se encontraran con el inicio de un procedimiento de devolución sin tener conocimiento previo de la existencia de las cantidades indebidamente recibidas se hizo para ayudar para facilitar la información la experiencia nos dice además que muchas de las personas

voluntariamente reintegran la cantidad que habían cobrado de más también se permite la devolución

en el supuesto de estar de acuerdo con la cuantía indicada

la justificación de la iniciativa dice que el envío de las cartas ha generado malestar temor

sinceramente les digo el malestar y el enfado se ha magnificado tanto por los medios de comunicación como por los representantes políticos que han pretendido esta situación para azotar al gobierno vasco en este caso por medio de las criticas a lanbide además utilizando un argumento y el contrario

hasta que una notificación previa al inicio de procedimiento que busca la devolución voluntaria de las ayudas cobradas indebidamente no se debiera de haber hecho de esta forma qué hubiera sido mejor comunicarles directamente el inicio del procedimiento de devolución creemos hubiera generado más malestar miedo y perjuicio a los y las perceptoras de ayudas

ha servido en muchas ocasiones para voluntariamente devolver las cantidades

no nos cansaremos de decir que el sistema funciona que el sistema de protección social que tenemos en euskadi es muy bueno pero evidentemente hemos mejorar la tramitación y el funcionamiento de lanbide lo hemos dicho hasta en la saciedad todo lo que suponga mejorar

pero reconozcamos también lo que se hace bien y las notificaciones previas cumplen con su objetivo notificar la existencia de la deuda con el número de expediente de inicio y la posibilidad de abonarlo voluntariamente además como decíamos con anterioridad pretenden facilitar la información a los y las perceptoras de rgi y pcv con carácter

estamos de acuerdo en seguir mejorando y la apuesta del gobierno es firme al respecto gure ustez erantzukizunez jokatu behar dugu politikariok

lo único que consiguen es seguir alimentando las posturas contrarias al mantenimiento del sistema de protección social que tenemos no buscan la mejora del sistema ni facilitar la información a los y las perceptoras de ayudas

evidentemente la labor de la oposición es controlar al gobierno mejorar con su acción el trabajo de aquel pero no olviden que el último fin

no todo vale con su actitud de hoy no persiguen la mejora del procedimiento que redundaría en beneficio de la sociedad buscan única y exclusivamente
el castigo al gobierno y el tiempo les dirá que se equivocan eskerrik asko arregi andrea erantzunen txandara pasatuz

esaten zen lanbide asumió la competencia sin medios informáticos humano recién incorporado esto provocó en lanbide una acumulación de tareas en la tramitación de solicitudes

el objetivo fue reducir los retrasos en la tramitación en dos mil trece la prioridad el cumplimiento plazos legales de la resolución ulertzen dugu

bueno efectivamente tenemos uno de los sistemas de protección más avanzado gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos vascos más avanzada no solo

de europa cuatrocientos treinta y cinco millónes de euros presupuestados

casi si no recuerdo mal vamos a alcanzar la cifra de cuatrocientos sesenta millónes de euros en los presupuestos

y eso obliga a cualquier gobierno especialmente obviamente al que tiene responsabilidades de consignar ese dinero que sale del esfuerzo de todos los ciudadanos

el velar porque el sistema sea justo sea solidario y funcione bien y eso a nuestro juicio y al juicio del partido popular y parece ser que también de los ciudadanos o de muchos ciudadanos

usted ayer mismo tenía un contacto con los ciudadanos por medio de estas posibilidades que dan las nuevas tecnologías y sabe perfectamente casi todas las preguntas que le dirigieron sobre

por lo tanto hay mucha preocupación en relación a cómo se gestiona este asunto en los ciudadanos porque yo creo que todos los ciudadanos somos muy conscientes de lo solidarios que somos

exigimos responsabilidad a aquel que tiene obligación de gestionar bien los recursos públicos y por cierto no es de recibo que se intente pasar esa responsabilidad a los ciudadanos

es ser eficiente y gestionar bien los recursos públicos y a la vista está que ustedes

señores del partido nacionalista vasco que son en este momento los que tiene la responsabilidad de gobernar y este gobierno

en dos años sí que es cierto que un año de

otro a ustedes ascendía a cincuenta y nueve coma ocho millónes de euros luego se nos dijo unas declaraciones en más de setenta millónes en una respuesta ayer se nos decía que ya eran sesenta y tres millónes y ya hasta hoy

respuesta parlamentaria por lo tanto nosotros le pediríamos que no hiciera dejación de su responsabilidad porque tiene una responsabilidad como gestor público responsable de la gestión de lanbide y porque lanbide es un servicio esencial para el cumplimiento de unos fines y unos objetivos muy determinados y más en estos momentos en momentos de crisis

también hay que darles una oportunidad porque se merecen una oportunidad y yo creo que este gobierno con lo que se está haciendo en lanbide con esa cifra de intermediación de un dos coma uno por ciento no está haciendo todo lo posible o lo que pudiera estar en sus manos

darles una oportunidad a esas personas y mire señora sarasua eso es legitimar el sistema poner de manifiesto las deficiencias y corregirlas y desde luego cuando hay un gobierno que no las corrige y no las subsana

y poner encima soluciones como hemos hecho el partido popular en esta iniciativa y en la iniciativa de la semana pasada que ustedes no quisieron ni entrar en el debate

consejera la señora zabaleta y decía muy alto y muy claro claro años anteriores hablaba de que el partido popular cronificaba la pobreza pero

objetivo del sistema y nos pusimos de acuerdo para modificar los requisitos de acceso a las prestaciones igual que también la revisión

los requisitos una vez que uno está dentro del sistema con el objeto precisamente de la empleabilidad y de conectar las prestaciones a la búsqueda

o por mucho que algunos ante la realidad tozuda de los datos que cada día estamos conociendo y que además

mayores esos datos de cobros indebidos o pagos indebidos verdad señor consejero depende donde pongamos el énfasis prefieren seguir mirando para otro lado

la labor de la oposición será o por lo menos

y allá también donde tenemos responsabilidades de gobierno porque entendemos

a poner de manifiesto esa realidad que usted comprobó ayer por medio de todas las preguntas que le formulaba

y tirar un tirón de orejas y dar un tirón de orejas a aquellos

en la gestión de lanbide que claramente no está cumpliendo

dónde está la rpt de lanbide si usted nos está diciendo que era algo urgente que era lo que daba legitimidad al sistema dónde está esa rpt esa relación de puestos de trabajo

si es que usted era el que nos decía que mejor hoy que mañana que mejor mañana que pasado si es que nos está diciendo eso continuamente usted sabe

mantenemos nuestra enmienda que creo que sigue poniendo deberes a este gobierno de todas aquellas cuestiones que están pendientes

efectivamente en este debate estamos hablando que es lo que pone en el orden del día

nos vamos a ceñir porque hay miles de personas interesadas en saber qué está pasando hoy en este parlamento y qué va a pasar en un futuro

y por eso mismo los socialistas queremos pasar de las palabras de contar los cuentos a los hechos y bueno insistimos en que la transacción con eh bildu es buena recoge las peticiones de las personas afectadas

y anoche me trasladaban su satisfacción y nos daban las gracias a los grupos que estamos intentando resolver un problema que ellos

que hay que pasar de contar lo que está ocurriendo para tomar decisiones y resolver eso que está ocurriendo que lo están generando ustedes las personas que están en este momento en el gobierno vasco decía la señora del partido nacionalista

que estamos haciendo un reproche al gobierno y un castigo al gobierno no señora arregi

nosotros no estamos haciendo eso nosotros estamos reconociendo las deficiencias de las administraciones públicas en este caso las deficiencias que están pasando en lanbide y entiendo que es tiempo de poner soluciones evidentemente pero usted no puede decir que nosotros estamos castigando al gobierno es el gobierno el que ha mandado por cierto

porque las notificaciones son otra cosa son un inicio de instrucción de un procedimiento que da derecho a una defensa legal y efectiva de las personas las comunicaciones no entonces es el gobierno el que manda esas diez mil cartas de forma masiva

en el foco de atención de todos los medios de comunicación a esas personas que algunas de ellas no saben ni lo que está pasando

no saben ni interpretar la carta que han tenido que solicitar ayuda eso es lo que ha pasado por lo tanto no pueden decir ustedes que somos los socialistas los que

para castigar al gobierno porque eso no es cierto el acuerdo que está transado con el grupo eh bildu que ustedes pueden leer da solución a un problema que ha generado el gobierno vasco que ahora mismo gestiona el partido nacionalista y que lleva dos años y nosotros le décimos

cómo se tiene que resolver ese problema y efectivamente el señor aburto reconoció en este parlamento el día seis de octubre a instancias del grupo socialista

tenía voluntad de reconducirlo además señora garrido usted nos puede reprochar lo que usted quiera pero sabe cuál es la realidad que lanbide está dando cobertura

que está sin trabajo producto de una reforma laboral que ha acabado su prestación de desempleo y los subsidios que no tiene cobertura del estado de españa del estado español

que nadie lo quiere cuestionar que los socialistas a diferencia de ustedes queremos tomar medidas por supuesto para protegerlo

desde luego hay que analizar y saber si existen deficiencias en este momento que corregir y en eso hay que debatir pero es que ustedes no han traído propuestas ustedes han traído otra cuestión

y lanbide no se ha creado para colectivos se ha creado para dar cobertura a personas a través de una ley la ley

que ustedes también debatieron y apoyaron y ustedes nunca han cuestionado

la tramitación de la renta de garantías y la prestación de complemento de vivienda en lanbide

al carro de un debate fácil poniendo en el foco a una serie de personas cuando

hablar de ello y son muchos miles de millónes de euros que se pueden

y precisamente utilizarla solidariamente con las personas que en este momento más lo necesitan que son los que están siendo víctimas de una larga crisis que ellos no han creado

porque hay que decir una cosa que las personas van a lanbide buscando un empleo y como no hay empleo no lo encuentran en la calle para vivir para vivir dignamente no pasar hambre necesitan

esa es la cuestión podría decirle mucho más pero entiendo que este debate tiene que ser responsable coherente y que lo único que vuelvo a insistir en la cámara que sería interesante que saliera de aquí algo aprobado para resolver el problema

y solamente de ustedes depende la responsabilidad del voto que quieran emitir por nuestra parte nada más y muchas gracias

legebiltzarburu andrea mire señora sarasua que ustedes vengan a pedir al gobierno que se excuse por haber mandado unas cartas informativas

ustedes que montaron lanbide de aquella manera por favor un poco más de seriedad es lo que tendrían que tener a la hora de criticar su situación porque de aquellos polvos

y que hablen de que el gobierno tiene que aclarar públicamente que la deuda ha sido generada por lanbide y no por fraude de los y las perceptoras ya me parece

si nadie hablaba de fraude esa iniciativa se debatió la semana pasada y por cierto decidimos no entrar en el debate porque no estábamos de acuerdo con las denuncias de fraude vertidas por diferentes representantes del partido popular me quieren explicar usted y la señora arrondo a qué viene hablar de fraude hoy ustedes son los únicos

mire estamos para mejorar el sistema el procedimiento y ustedes evidentemente hacer oposición pero no todo vale en política se han pasado de frenada

de forma previa al inicio del procedimiento la existencia de una cantidad indebidamente recibida dónde y quién habla de fraude aparte de ustedes

y se lo he preguntado en mi primera intervención y no me han contestado no hacer la comunicación previa

insisto flaco favor le están haciendo a los y las perceptoras de rgi y pcv porque lo único que buscan

no están velando por el bien de las personas que reciben las ayudas estamos de acuerdo en la mejora del funcionamiento de lanbide lo hemos dicho una y mil veces y en ello estamos desde el principio se ha primado que las personas

francamente mal se está primando insisto en que

se hagan en plazo y nosotros tenemos claro que no hay fraude sí

disfunciones la señora garrido hablaba de irregularidades y disfunciones y muchas veces ocurren porque los propios perceptores y perceptoras no comunican debidamente o en plazo las modificaciones de las condiciones que dan derecho

de lanbide mala gestión de lanbide decía la señora garrido por supuesto que todo es mejorable el procedimiento es mejorable pero

en cuanto a que la apuesta en marcha de ese lanbide fue puesta

le recuerdo si la rpt las aplicaciones informáticas ha hecho mención que había mencionado el señor consejero

cuando se puso en marcha lanbide desde el inicio que siempre nuestro grupo defendió que se hiciera de forma y de aquellos polvos insisto estos lodos no se hizo caso se cogió todo y así se puso en marcha de forma que al inicio ha sido un auténtico

estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor maneiro que hablaba que las deficiencias de lanbide se están aprovechando por algunos para hablar de fraude totalmente de acuerdo

como hacen la señora arrondo y la señora sarasua en su enmienda transaccional no

con esa enmienda transaccional estamos mejorando va lento y todo lo que suponga mejorar evidentemente tendrá el apoyo de nuestro grupo como así ya también reconoció

hitz egingo dugu el control y quiero que quede claro

existe y se ejerce en lanbide hoy mismo aprovechando una contestación del gobierno de ayer se habla

de que ha habido ochenta y seis millónes de euros de cobros indebidos de los cuales

recuperados diecisiete millónes y el gobierno continúa

recuperar el resto de la cantidad por lo tanto el control existe insistimos y ya está por debajo de la propia cantidad que el consejero aburto respondió a varias de las preguntas que se le hicieron en este parlamento que hablaba de setenta y dos millónes y ya estamos en sesenta y ocho coma ochenta y ocho por supuesto que es una cantidad grande
y que deberá seguir el gobierno arregi andrea amaitzen joan mesedez por medio de lanbide realizando los

gracias presidenta lehendakari consejero señorías para situar la cuestión de una forma simple debo señalar que la ley de arrendamientos urbanos del año mil novecientos noventa y cuatro estableció un modelo proteccionista a favor del arrendatario

llevó al régimen del libre mercado los contratos de arrendamientos de los locales comerciales esta ley la de mil novecientos noventa y cuatro regulaba

a los distintos contratos de alquiler en función del tamaño del negocio y del impuesto sobre actividades económicas que en aquel momento se venía pagando por las pequeñas empresas en esta ley de arrendamientos urbanos de mil novecientos noventa y cuatro se aprobaron moratorias de cinco diez quince y hasta veinte años

y del importe del impuesto de actividades económicas en concreto para los locales comerciales de menos de dos mil quinientos metros y con un impuesto

a los contratos de alquiler que hasta ese momento estuviesen firmados y luego en el tiempo si van pagando actualizaciones iguales al ipc bien pues este plazo esta moratoria finaliza este treinta y uno de diciembre dos mil catorce por tanto a uno de enero del año dos mil quince los titulares de negocios tendrán que firmar nuevos contratos de arrendamiento y tendrán que hacer las nuevas negociaciones

y en la que hay dificultades de acceso a la financiación de las empresas esto supone que muchas empresas comercios negocios

se están viendo forzados a negociar un nuevo contrato de alquiler con un más que probable incremento de la renta lo que para muchos dado el actual contexto de crisis económica y además con la caída del consumo familiar más las dificultades como decía antes de financiarse podrían verse muchos de esos negocios o titulares de esos negocios

al cierre definitivo de esos establecimientos tan arraigados y consolidados

y supondría también tener que acabar con un significativo número de puestos de trabajo que la actividad comercial está generando es verdad que podemos estar

los intereses del arrendador que tiene su derecho a recuperar la posesión de su inmueble y conseguir la máxima rentabilidad posible de la propiedad

de continuar con su actividad económica en unas circunstancias que hagan su empresa viable

quedó compuesto equilibrado de manera aparentemente suficiente

que ahora el treinta y uno de diciembre acaba entendemos que el interés del propietario no puede sacrificarse infinitamente estamos de acuerdo el sentido de nuestra propuesta de la propuesta del grupo socialistas vascos era regular en principio un periodo transitorio hasta que el país retome un punto de moderado crecimiento capaz de permitir un aterrizaje suave de los alquileres a los que se va a privar de la protección legal

sobre unos parámetros interesantes tanto para el arrendatario como para el arrendador

no era fácil saber o acertar en qué momento económico podríamos encontrarnos

por lo tanto era muy difícil prever muy difícil establecer que después de veinte años íbamos a pasar por la situación económica en la que nos encontramos así el comercio minorista es uno de esos sectores más afectados por la crisis

esta disposición transitoria de la ley de arrendamientos urbanos de mil novecientos noventa y cuatro

la que ha tenido una caída en su actividad del uno coma seis por ciento desde principios de este año dos mil catorce desde este ejercicio en el año dos mil trece nuestra comunidad autónoma euskadi encabezó en mayor descenso de la actividad del comercio minorista con un descenso en ventas del seis coma uno por ciento

en cuanto a ventas en el año dos mil trece cayó el uno coma cinco por ciento y si a esta situación le añadimos el hecho de que en el último observatorio de ikusmer un ocho por ciento de los comercios en euskadi es decir

a mil novecientos ochenta y cinco pues en fin se encuentran todos ellos bajo la moratoria legal a punto de finalizar el treinta y uno de diciembre por lo tanto una situación dejémoslo en un adjetivo complicada ante este escenario

tratamos con la iniciativa socialista de hacer ver que se va a producir una situación que como mínimo requiere de una actuación de los poderes públicos

porque al eventual cierre o traslado de estas empresas o comercios consolidados durante veinte o treinta años

con la aparición la instalación la implantación de otros nuevos negocios porque la tasa de mortalidad de las empresas de nueva creación

tanto en españa como en euskadi se está llegando a hablar incluso por los expertos o por al menos los medios

en estos aspectos se habla de una media de un setenta por ciento ochenta por ciento de negocios de actividades que no llegan a cumplir los cuatro años o los cinco años desde su implantación

y compleja por tanto se va a producir sí o sí un cierre importante de empresas consolidadas y que son viables al día de hoy es decir que son establecimientos

esta no implantación de nuevas empresas cuando se cierran las anteriores por la cuestión de la renta pues puede hacer que el sistema tenga verdaderas dificultades y no encontramos además no solamente con un problema económico que es lo que queríamos hacer ver en nuestra iniciativa

de índole social y también tiene su alcance en el ámbito urbanístico porque los cierres o la no continuidad de la actividad comercial

gravísimo problema pero también puede llegar a ocasionar al localizarse esos comercios bien implantados desde hace

puede ocasionar como decía una deslocalización de comercios y por lo tanto una desertización de la actividad comercial en nuestras calles en nuestros pueblos y en nuestras ciudades

nuestra iniciativa original la de los socialistas vascos pretendía esta modificación de la ley veintinueve barra mil novecientos noventa y cuatro de veinticuatro de noviembre de arrendamientos urbanos

con una redacción muy similar a la que nuestros compañeros en el senado habían planteado también con una proposición de ley que no fue

por los votos contrarios de la mayoría del partido popular pero

en qué parámetros y con qué indicadores podría establecerse ese régimen transitorio porque señorías a nuestro modo de ver el mantenimiento del empleo debe ser

en las circunstancias económicas a las que nos enfrentamos hoy en día el descenso del consumo de las familias esa crisis económica esa falta de financiación de las empresas y las altas tasas de desempleo son

y como quiera que este primer punto de nuestra iniciativa no lograba acuerdos o los consensos suficientes para ser aprobada sí nos parecía necesario apoyar la enmienda transada

consensuar con el mayor acuerdo posible la intervención del gobierno vasco en este asunto que va a traer problemas emplazando al gobierno a presentar junto con el sector después de analizar o diagnosticar

de esas rentas antiguas en euskadi poder plantear las medidas de común acuerdo con el sector las medidas que puedan paliar los efectos perniciosos

por eso apoyamos esa propuesta de pedir al gobierno vasco que analice junto con las organizaciones representativas del sector comercial y con su colaboración la cuestión de actualización de esas

nosotros planteábamos en nuestra iniciativa original también la inclusión de una línea de crédito ico para ayudar al traslado la reforma o la adaptación de las empresas que se vea afectadas por ese fin de la moratoria y es verdad que en el plan integral

que tiene el gobierno de españa entre las líneas de intervención está la del apoyo financiero con una línea ico de nueve millónes de euros para ofrecer financiación al sector nosotros entendíamos que también el gobierno vasco debe colaborar en generar unas líneas de financiación

seguramente los propios agentes del sector plantearán al gobierno que es necesaria estas líneas de financiación con toda probabilidad

que la financiación para ese traslado y reforma de los locales se va a dar se va a plantear y lo importante es que se acuerden las acciones y las medidas a promover dirigidas

gobierno vasco junto con el sector sea la realización posible de un programa de protección integral

en el que la rentabilidad económica inherente a esta actividad no impida el mantenimiento y fomento de la riqueza patrimonial de las ciudades y pueblos de euskadi que representa la actividad comercial

y los agentes sociales del sector comercial deben intervenir en elaborar de forma consensuada un programa de protección integral del patrimonio comercial histórico porque hay que proteger las actividades comerciales de proximidad y fundamentalmente aquellas que llevan arraigadas y asentadas en nuestras calles y en nuestras ciudades desde hace más

de veinte o treinta años y que han podido mantener ese negocio en tiempos malos en tiempos muy duros y en tiempos de bonanza por tanto bien implantados bien asentados y viables y creemos que es necesario ese programa de actuación para evitar sobre todo la desertización de nuestras calles

vida y vitalidad a nuestras calles y no solamente vida y vitalidad en lo económico sino que también promueve un valor porque están revalorizándose inmuebles y también el dominio público porque luego eso contabiliza en los índices para las tasas de ocupación de dominio público por lo tanto

algo más que pura rentabilidad económica tiene un valor social por la cuestión del empleo que genera y tiene además un valor urbanístico

para nuestras calles para nuestras localidades y para nuestras ciudades y por lo tanto eso hay que protegerlo hay que mimarlo y hay que cuidarlo y yo espero que realmente la

de protección integral del patrimonio comercial y si no llega a ser el caso porque las medidas que se pretenden implantar tienen que ser medidas muy cortoplacistas porque el plazo de la moratoria acaba el treinta y uno de diciembre los socialistas insistiremos en esta cuestión

del patrimonio histórico comercial de nuestras ciudades es un tema importante es un tema que

tiene su importancia y su valor y en ello vamos a seguir insistiendo por lo tanto nos hemos a esa enmienda transaccional a la propuesta que más apoyos concitaba esperando que en la misma de verdad las organizaciones comerciales las organizaciones del sector comercial vean al menos subsanadas

en los medios de comunicación y en la calle porque el tema

que el gobierno vasco sepa acertar en las medidas que se plantean porque son las medidas que el propio sector estará forzando al gobierno a plantear

espero que la enmienda transaccional tenga los máximos apoyos posibles porque se trata de familias que están hoy con la persiana levantada

la justificación de la iniciativa la vigente ley de arrendamientos urbanos de mil novecientos noventa y cuatro

de arrendamientos de mil novecientos sesenta y cuatro por un plazo de veinte años a contar desde la entrada en vigor de la actual ley con algunas excepciones muy tasadas

se cumple ese plazo argumenta en la exposición de motivos el grupo socialista

social y urbanístico y continua diciendo que el escenario al que nos conduce la supresión de la prórroga en aquellos contratos de arrendamiento adquiere una dimensión tal que requiere la inmediata actuación de las instituciones para garantizar que la transición de un modelo a otro se produzca en cualquier caso

para la supervivencia del tejido empresarial y especialmente del comercio de calidad y de proximidad del pequeño comercio con personalidad propia y a partir de ahí

entre ellas la más conflictiva y la que no contaba creo con el apoyo de ningún otro grupo de esta cámara no al menos con el nuestro proponía

de urgencia la disposición tercera de la ley y la instauración deun régimen transitorio de estos contratos de arrendamiento de local de negocia de renta antigua que conlleve una actuación de las rentas que garantice

entre las partes etcétera a pesar de que la iniciativa original podemos decir que ha desaparecido y que finalmente se ha firmado una transaccional mucho más

poner sucintamente las razones por las cuales nosotros nos oponíamos a la instauración de un nuevo régimen transitorio básicamente son

apuntar razón primera por razones de seguridad jurídica desde hace veinte años se sabía que llegaría el vencimiento de la moratoria y que ello tendría una serie de

que han sufrido pacientemente durante décadas los propietarios de los locales y obviamente el incremento posterior de las rentas que pagan los arrendadores tras estar pagando durante años cuantías ridículas sería

pacientemente nada más y nada menos que durante veinte años y porque es justo que esas expectativas se cumplan y porque es justo y el fin de la moratoria llegar a decir que sería

en los alquileres existentes cuando se ha gozado de una prórroga de veinte años para poder adaptarse progresivamente a las nuevas rentas

demasiado sentido por otro lado nos parece muy mala idea la presentación de iniciativas que tienen como objetivo la ampliación constante de las moratorias o plazos legales como ya sucedió recientemente con la iniciativa presentada en relación a la modificación

y urbanismo razón segunda porque supondría premiar al mal empresario desde hace veinte años se sabía que esto ocurriría y por tanto me parece

habiendo tenido tantos años para haber gestionado y planteado una solución a ese posible problema bien por vía de pacto con el propietario

un emplazamiento alternativo de hecho esta medida es en parte una forma de corregir injusticias ya que hay locales de similares características en los que se llega

de la renta antigua razón tercera

dinámico de rentas contrariamente a lo que se dice los arrendamientos están bajando rentas y por tanto no es cierto globalmente que no puedan pactar alquileres razonables

siempre es mejor para el comerciante o para el empresario pagar menos o no pagar nada

fuera del mercado de hecho según el último barómetro de ikusmer que el propio grupo socialista cita entre dos mil doce y dos mil trece se produjo una reducción media del alquiler del casi dieciséis por ciento es decir un punto porcentual más de reducción

dos mil once en dos mil trece más del cincuenta por ciento de los comercios minoristas consiguieron reducir el precio del alquiler de su local algún dato más en dos mil trece el cuarenta y dos por ciento de los locales comerciales estaban en régimen de alquiler el diecisiete coma tres por ciento de los comercios minoristas en régimen de alquiler se clasifican como comercios cuyo régimen de alquiler es de renta antigua sobre el total del comercio minorista vasco supone el ocho por ciento de los comercio sin embargo ya en dos mil doce

con renta antigua o bien había iniciado el proceso con el propietario para renegociar el contrato o bien ya había finalizado el proceso razón cuarta

veremos cerrar establecimientos tradicionales que se sustentaban no en su buena gestión

sino única y exclusivamente en las rentas bajas que les permitían sobrevivir y nos parece que esto es digamos mantener determinados comercios de manera artificial y esto en el corto plazo puede estar bien pero en el medio y en el largo plazo no tiene

es cierto que algunos locales tendrán que cerrar los menos seguramente pero también es cierto que con la finalización de la prórroga se generará una mayor estabilidad y se facilitará la consolidación de los principales ejes comerciales de las ciudades

algunas más actualización de la economía española hace unos días falleció miguel boyer

reforma que empezó en el año mil novecientos ochenta y cinco

de la economía sería paradójico que en lugar de rematar su trabajo ahora la puntilla sí pensamos que es necesaria

es cierto que no podemos dejar de lado al comercio minorista es por eso que en nuestra enmienda apoyamos la ampliación y mejora de condiciones de la línea ico minorista con el objetivo principal y esto yo creo que es lo más importante del reacondicionamiento y modernización de los locales de los comercios minoristas urbanos

por la finalización del plazo de moratoria establecido en la disposición

de la ley pensamos que este debe ser el camino modernización actualización de los comercios existentes para que no de manera artificiosa o artificial puedan seguir existiendo porque efectivamente son rentables

y mantienen o crean empleo de ahí por lo tanto nuestra enmienda en la que proponíamos instar al gobierno de españa a la ampliación y mejora de las condiciones de la línea ico minorista y de ahí que instáramos también al gobierno vasco a que en colaboración con las diputaciones forales ayuntamientos y agentes sociales implicados elaborase

un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico que ponga en marcha acciones en defensa de la actividad comercial y ayude a la conservación del paisaje comercial bien finalmente como decía al principio la iniciativa original ha desaparecido porque no

necesarios y se ha firmado una transaccional que a nosotros nos parece mucho más razonable y que creo que como el resto de grupos vamos a apoyar

eventuales medidas que podrían incluir un programa de protección integral comercial histórico ahora habrá que ver efectivamente qué medidas concretas plantea el gobierno nosotros abogamos por actuaciones modernizadoras y de apoyo porque pensamos que es lo mejor para todos y es lo mejor también para el comercio minorista es lo que más les interesa esto es lo que nosotros defenderíamos por lo tanto actuaciones modernizadoras y de apoyo lo que no nos parece razonable

pan para hoy pero hambre para mañana es poner en marcha o defender posturas paternalistas o proteccionistas de intentar salvar a cualquier precio

a día de hoy no puedan tener futuro el asunto es modernizarse para que los comercios tomen las medidas pertinentes se puedan mantener

comercios posibles se mantenga empleo se cree empleo y mejore en general la situación de la ciudadanía en todo caso esas medidas las observaremos

en todo caso lo que se propone en la transaccional finalmente firmada nos parece mucho más razonable de lo que se proponía inicialmente y por eso votaremos a favor de ella

la ley de arrendamientos urbanos de mil novecientos noventa y cuatro ley socialista impuso una moratoria de veinte años

de veinte años para la finalización de los contratos llamados de renta antigua efectivamente fue una decisión que tomaba

y para evitar los daños que podía ocasionar en el pequeño comercio efectivamente se estableció una prórroga en los contratos de veinte años

por el partido popular que solicitó en aquel momento mayor flexibilidad

a los pequeños comerciantes en todo caso el gobierno del partido popular en el año mil novecientos noventa y nueve

promovió una revisión de esa ley que permitió a muchos comerciantes llegar a acuerdos con los propietarios

y aumentar la prorroga de permanencia en esos locales comerciales que hoy

partido socialista quiera enmendar su propia ley y sus propias decisiones de aquel momento es verdad que nos parece curioso pero lo que nos parece más curioso todavía

en el último momento prácticamente a un mes a dos meses de que

entre en vigor la nueva situación el uno de enero de dos mil quince no

el planteamiento inicial de la propuesta socialista que nos ha traído a este debate además

de la propuesta en relación con el número de afectados se ajusten a la realidad no lo creemos es verdad que hemos conocido noticias

ha llamado la atención y ha tratado de alertar sobre los problemas que podían derivarse de la finalización de la prórroga pero los representantes del sector comercial

esos datos a la hora de analizar la repercusión de la finalización de la prórroga ni mucho menos no creemos que sea cierto ese horizonte negro que se dibuja en la propuesta

creemos que no creemos que eso es falso los comerciantes en euskadi y en el conjunto de españa hace ya mucho tiempo

tomaron sus decisiones hicieron los deberes y se han preparado y adaptado a la nueva situación yo creo que con tiempo

en la intervención anterior estamos ante un problema que afecta ya a muy pocos comerciantes los datos de las propias asociaciones reflejan que estamos hablando de que menos del dos por ciento de los comerciantes se puedan ver en este momento afectados de una manera negativa o que suponga algún tipo de riesgo

autónomo comerciante pequeño comerciante pequeño empresario que este en una situación de riesgo en este momento pero es verdad

nuestra opinión no se puede hablar como se dice en la exposición de motivos

no es razonable hablar de brusco cambio en las reglas de juego cuando estamos hablando de una prorroga de veinte años

adecuar los negocios a la nueva situación que ha permitido además acordar con los propietarios y buscar salidas razonables

de este tiempo cómo se puede hablar además que se plantee esto por el grupo socialista justo quien planteó

que hace falta no sé si mucho valor en todo caso poca responsabilidad para plantear

desde luego como le decía estamos convencidos que ya tomaron sus propias decisiones y además tomaron las decisiones precisas para afrontar de la moratoria estamos por tanto hablando de un efecto muy limitado pero en todo caso desde el partido popular como les decía queremos ser

y por eso nuestra enmienda de totalidad planteábamos como se ha dicho aquí como se ha recogido finalmente también en esa

una atención específica a quienes en este momento puedan verse afectados planteábamos ayudas concretas planteábamos ayudas concretas que desde el gobierno vasco se pueden prever para situaciones de alto riesgo en todo caso creemos

que esta propuesta que recoge la enmienda de transacción creo que es adecuada nosotros vamos a votarla a favor vamos a votar a favor

el gobierno tome medidas para prevenir y apoyar

la actividad comercial especialmente en los cascos históricos y en los centros de las ciudades creo que eso es

que no ha hecho lo que tenía que hacer que en este momento se pueda poner en quiebra o en discusión

y efectivamente creo que el pequeño comercio hoy necesita medidas de otro calado este no es el problema hoy de los comerciantes en el país vasco este no es el problema los comerciantes especialmente los comerciantes de los centros de las ciudades y de los cascos históricos necesitan

dinamización comercial para que esos centros de los cascos urbanos vuelvan a ser polos de atracción comercial en todo el país vasco

en este caso venir de la mano de planes específicos y por eso

un plan específico de estas características en todo caso anunciarles que mi grupo una vez que se ha retirado de la propuesta el planteamiento de nuevas moratorias y de revisión de la ley todo lo que son

de apoyo y como se plantea en la propuesta

de comercio en apoyo de ese tejido y de la actividad comercial en los cascos históricos especialmente

en aquellas zonas con especial valor histórico y comercial creemos que es de recibo y por eso

tuvimos conocimiento de esta proposición no de ley la verdad es que

o la cuestión ya la conocíamos pero no habíamos detectado el problema de todas maneras nosotros lo que nos dispusimos fue a intentar

si lo que se planteaba era correcto creíamos necesario ser lo más precisos posible no crear alarmas al menos en euskadi desde ese punto de vista una primera comprobación que nosotros

por esta cuestión y lo que nosotros nos encontramos es que el número de establecimientos con renta antigua en euskadi según ikusmer como ha comentado la señora corcuera es del ocho por ciento por tanto estamos hablando de dos mil ciento sesenta establecimientos y no

que se cita en preámbulo de la proposición no de ley

pensamos que es un dato que había que ajustar para básicamente no generar ningún tipo de alarma porque si trabajamos con datos que no son ciertos pues lógicamente podemos llegar a conclusiones erróneas por otro lado

a consultar con el sector y con las asociaciones del sector para recabar su opinión acerca de esta cuestión y

en nuestra masa asociativa no hemos tenido ningún caso en el que se nos haya trasladado preocupación les venimos ayudando a regularizar la situación

no conocemos ningún caso que estando en esa situación no haya logrado renegociar su alquiler gipuzkoa

nada hay que corroboren esos rumores la asociación de hosteleros de gipuzkoa

asociados solo dos están en situación de no haber renegociado el alquiler y estamos prestando las ayudas correspondientes

la asociación ha informado esto no es literal sino que lo digo yo ha informado a sus asociados en su publicación del mes de octubre de esta situación

lo desee sin embargo por el momento no ha surgido ningún caso bilbao dendak gasteiz on y donostia shop

ha renegociado ya su situación con los propietarios no ha llegado a bilbao dendak

por tanto nosotros lo que concluimos es que empresarios autónomos del sector se han preocupado durante los últimos veinte años en velar por solucionar la situación de sus empresas y de sus tiendas

han dado cobertura a sus asociados y les han ayudado y lo siguen haciendo por resolver cualquier situación

por tanto nos da la impresión y tenemos la sensación de que se están trabajando con cifras incorrectas y que quizás esté generando una alarma que

de todas maneras por aquello de otorgarle el beneficio de la duda y por si pudiera existir algún tipo de situación que escapa incluso al conocimiento de todas las asociaciones representativas nosotros hemos aceptado

tal y como dice en la enmienda que hemos transaccionado que

no ya de una simple consulta más o menos informal que hemos desarrollado nosotros sino algo un poco más sistematizado en ese sentido es lo que ya se ha leído aquí

junto con el sector la cuestión de la actualización de las rentas antiguas que en colaboración con ellos lo analice y presente en el plazo de un mes

nos parecía razonable el que se impusiera y que se estableciera un plazo de un mes eventuales medidas igual ninguna pero bueno

más allá de las impresiones que podamos tener nosotros como grupos parlamentarios que pueden ser más o menos acertadas por tanto de alguna manera

la existencia de un problema de dimensiones incontrolables y que puede provocar

qué situación tan complicada al menos en lo que se refiere a euskadi en relación al segundo punto el ico ya se ha hablado ya ha comentado el señor maneiro que existe un ico minorista

la verdad es que nosotros no teníamos muy claro a qué se refiere

que incluso el grupo proponente tampoco lo tenía muy claro tanto aquí como en junio en el debate que se produjo en el senado

los ayuntamientos que incluye evidentemente a los comercios comercios que puedan constituir patrimonio histórico pues más o menos ya existe cualquier ciudad que se precie lo tiene

de nuestras ciudades bueno yo creo que también existen programas de ese tipo sin embargo también por aquello de

el beneficio de la duda en la enmienda que hemos transaccionado incluimos de una manera explícita

del plan o del programa de protección integral del patrimonio comercial histórico a efectos de que también lo analice el gobierno vasco con el sector nosotros no hemos detectado por el sector una demanda de ese tipo pero puede ser que

en torno a una mesa lo vean como algo necesario pero

ese análisis el gobierno vasco y el sector y se podría incluir pero pedimos sobre todo un análisis por parte del sector junto con el gobierno vasco eta euskaraz esaten den bezala gero gerokoak eskerrik asko

sí gracias presidenta y brevemente aquí se planteaba por parte de upyd que no veía el porqué de la moratoria y ya ha dado el perdón de la propuesta para que

en la ley de arrendamientos urbanos y ha dado sus explicaciones yo le he dado las mías en un principio por qué había ese planteamiento de ese periodo transitorio

a ver si suena la flauta por otro lado comentaba el partido popular

promueven los socialistas como que no quedaba bien como que era una falta de responsabilidad o poca responsabilidad supone el planteamiento de una reforma pero aquí qué pasa que en este país hacemos una ley y

eterna en fin yo creo que las cosas y los tiempos van cambiando y veinte años después este país ha cambiado y ha cambiado españa ha cambiado euskadi

veinte años son veinte años no es ni cuatro ni cinco meses un periodo breve de tiempo son veinte años es decir que la cosa

cuando se dice que este no es el problema hoy de los comerciantes en euskadi yo les digo

de algunos comerciantes en euskadi y si no no salen los medios de comunicación

ni una loca ni dos locos a decir que tienen un problema

y lo tienen ustedes en medios de comunicación escrito en prensa en radio en televisión este tema se trató

no nos estamos inventando un problema este problema existe y quizás lo bueno de la enmienda a la que hemos llegado en un acuerdo

de la iniciativa que ha tenido el grupo socialista es que de este tema hemos hablado y es posible en un mes por el acuerdo de la enmienda de transacción

analizar las afecciones del problema y darle solución

lo importante y ese es el valor que tiene la iniciativa socialista planteada

con el apoyo unánime de esta cámara por lo tanto creo que hoy la acción política de impedir

de incentivar la economía y de incentivar la actividad comercial en nuestras ciudades creo que eso hoy lo logramos por acuerdo unánime por lo tanto bienvenida sea la iniciativa y bienvenido sea el acuerdo y si para ese acuerdo hay que reformar o plantear la reforma de una ley que hicieron los socialistas en el año mil novecientos noventa y cuatro se plantea señor oyarzabal

yo creo que la actividad comercial además de proximidad

no solamente aporta redistribución y equilibrio económico es que es además también un factor de cohesión y de convivencia de estructuración de ciudad creo que estamos a todos apostando por un modelo de ciudad cohesionado donde no tengamos ciudades exclusivamente residenciales en las que vayamos a dormir

y nuestras zonas las urbanas en nuestras localidades sean zonas de convivencia y que haya actividad comercial

que temas como este que hoy hemos planteado se resuelvan seguramente los que hemos planteado con anterioridad también y los que vendrán también serán importantes para que esa actividad se siga promoviendo pero era necesario hoy contar aquí que ese problema sí puede generar una determinada desertización de la actividad comercial

estábamos muy preocupados por esta cuestión y que esperamos que no se produzca porque con rentas antiguas o sin rentas antiguas estamos viendo en nuestras ciudades desaparecer comercios

muy arraigados comercio tradicional que era clave en nuestras ciudades

enseña y estandarte de cómo eran nuestras ciudades y ese comercio está desapareciendo y si no

que sí que desaparece por lo tanto si esta medida esta enmienda puede en cierto modo apaciguar y moderar esa desertización también será y en ese afán de adoptar unas medidas cortoplazistas porque necesitábamos que este tema se resolviera antes de finalizar el mes de diciembre de este año dos mil catorce bienvenida sea la transacción esperamos de verdad que ojalá señor oyarzabal sean pocos

ninguno el comercio que tenga que desaparecer o echar la persiana por esta cuestión de las rentas antiguas esperemos que no sea ninguno pero sabe qué pasa

que sí está preocupada en esta labor de la renta antigua y que ve que mañana que a treinta y uno de diciembre o a uno de enero tendría que echar la persiana

hoy con lo que vayamos a aprobar con esa enmienda transaccionada bienvenida sea la acción política muchas gracias

gracias señora presidenta mire

pero yo llegué a este parlamento hace ya muchos años casi cuando empezaba esta prórroga esta moratoria de los locales comerciales

discutiendo con la consejera socialista rosa díez porque ella defendía la implantación de grandes centro comerciales defendía todas las políticas contrarias al pequeño comercio defendía todas las política que ha hecho muchísimo daños a los pequeños comerciantes yo

que durante quince años solo ha traído a esta cámara medidas en contra del pequeño comercio pero le voy a decir una cosa mire

los propios representantes del sector gasteiz on en vitoria la

los representantes del sector no a quien se refiere usted con ese recorte de prensa los representantes del sector comercial

y que representan además a los comerciantes del casco histórico de las ciudades

y que han limitada exactamente el problema porque ya han encuestado a sus propios asociados además de reconocer que el cuarenta y cinco por ciento

aproximadamente están en alquiler el resto son comerciantes propietarios del local han presentado un cuarenta y dos por ciento creo que la cifra es

está en este momento en forma de arrendamiento el noventa y ocho por ciento ya había resuelto su situación en relación con la renta antigua no es cierto que

hace treinta años estén ahora abocados al cierre oiga yo abrí comercios hace veintiocho años

ya tenían actualizadas sus rentas oiga que estamos hablando de que aquí los comercios que hoy están pagando cincuenta euros cien euros treinta euros cuando al lado el comerciante de al lado tiene que también llegar a final de mes pagar a sus empleados y pagar a proveedores pagando dos mil euros mil quinientos dos mil quinientos tres mil treinta veces más de al lado eso con veinte años de moratoria en el prórroga

supondría efectivamente cambiar las reglas de juego en el último minuto de partido

han tomado sus propias decisiones la mayoría de comercios se ha adecuado a la nueva situación

ponga en marcha medidas de apoyo para la revitalización de la actividad comercial en los centros urbanos y en los cascos históricos de las ciudades por supuesto que sí en eso estamos de acuerdo por eso nosotros vamos a votar la iniciativa oiga pero no apunte el tiro de manera equivocada su justificación no se sostiene ni los datos que aporta son datos reales ni la solución que inicialmente aportaba era la solución adecuada usted como muy bien ha dicho

a una enmienda de transacción que plantea en sus justos términos lo que creemos que hay que hacer primero analizar exactamente cuál es la situación y a partir de ahí

nos diga qué va a hacer para adecuar y apoyar a quienes en este momento necesiten ayuda

nosotros entendemos que hay que hacer no favorecer que se perpetúe en el tiempo la competencia desleal de aquellos que no han sabido asumir
y tomar sus propias decisiones nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna casanova zurea da hitza

con esta iniciativa lo que pretendemos es que este parlamento inste a las diputaciones forales y al gobierno vasco a abrir una amplia investigación

profunda para analizar el funcionamiento interno y las responsabilidades tributarias de las cajas de ahorro vascas en el pasado las retribuciones y los gastos de representación

todo ello con el objetivo de despejar cualquier duda en relación al cumplimiento escrupuloso de la legalidad por parte de las entidades financieras y de quienes las dirigieren si se descubrieran irregularidades o cualquier tipo de fraude incluido el fraude fiscal se tomarán las medidas necesarias para depurar todas las responsabilidades que correspondan esto es lo que nosotros pretendemos que este

apruebe por qué pedimos esto cuando supuestamente no tenemos datos contrastados que nos posibiliten afirmar y asegurar que la gestión de las cajas de ahorro vascas se produjeron

o ilegalidades bien por parte de las propias cajas bien por parte de las personas que durante años las dirigieron pues porque en los últimos tiempos

irregularidades o ilegalidades cuáles son estos hechos bien hace unas semanas estalló el escándalo de las tarjetas de crédito opacas

y directivos de caja madrid y bankia en restaurantes viajes hoteles ropa alcohol joyas hoteles peluquería

y dos mil doce hablamos por lo tanto de un verdadero saqueo de dinero público llevado a cabo por los representantes del partido popular el partido socialista obrero español

y comisiones obreras en caja madrid y en bankia

de los directivos durante los últimos cuatro años las retribuciones repartidas en el seno del comité de dirección de caja madrid ascendieron a setenta y uno millónes de euros por cuantías variables que en muchos casos superaban los dos millónes de euros por ejercicio

conocidos han causado asombro y perplejidad en los ciudadanos que asisten abochornados y absolutamente indignados día sí y día también a nuevos casos de corrupción que se acumulan y se multiplican y ancho de todo el país y todo esto mientras se desahucia y se impulsan recortes sociales por cierto lo que los ciudadanos no quieren son lágrimas de cocodrilo a posteriori ni peticiones de perdón

y verbalizados por distintos dirigentes políticos lo que la ciudadanía quiere es transparencia diligencia y acción que no se cometan más irregularidades que no se produzcan más casos de corrupción y que se investigue hasta

posibles casos de irregularidades ilegalidades o cualquier tipo de fraude esto es lo que la ciudadanía quiere en definitiva lo que la ciudadanía quiere y nosotros también pedimos es que los corruptos vayan a la cárcel y devuelvan cuanto antes el dinero que nos han robado esto es lo que quiere upyd que se produzca en el país

o en bankia en las cajas de ahorro vascas pues bien respondo el hecho de que las cajas de ahorro vascas como todas las demás cajas de ahorro

que las parasitaron provocando con esa politización que solo upyd el hundimiento de muchas de ellas y porque está perfectamente demostrado que muchas de las decisiones que se tomaron en los órganos de gobierno de las distintas cajas de ahorro se tomaron previamente en las sedes de los distintos partidos políticos que las ocuparon tomando dichas decisiones con el único objetivo de defender sus propios

o incluso el lucro personal de sus representantes en lugar de tomar decisiones profesionales todos recordamos la financiación de proyectos inviables la condonación de deudas a partidos políticos

indemnizaciones millónarias es decir un verdadero saqueo a las arcas públicas y porque se han producido abusos en otras cajas de ahorro que upyd

o denuncias o poniendo los hechos en manos de la fiscalía bien sea en caja navarra caja segovia caja madrid bankia caja burgos o algunas otras

del partido popular en la comisión de hacienda afirmaba recientemente en el congreso de los diputados cuando estalló el escándalo y se conocieron los datos de este desfalco

si existieran indicios de delito o de irregularidades fiscales relacionadas con el uso de tarjetas opacas en otras cajas de ahorro distintas a caja madrid la agencia tributaria

las haciendas vascas investiguen estos hechos en relación a las cajas de ahorro vascas no pasa nada por investigar y poder

en otras partes de españa ya digo porque los que ocuparon los órganos de dirección de las cajas de ahorros de aquí son básicamente los mismos que los que ocuparon los órganos de gobierno de las cajas de ahorros de allí o al menos

coincidentes y porque la propia agencia tributaria llegó a anunciar la apertura de una investigación al respecto y porque el propio gobierno de españa

por si hubieran podido cometerse los mismos delitos o delitos semejantes y esto también me parece importante el propio gobierno de españa señaló que se investigarían empresas para comprobar si los mismos delitos pudieron haberse

no tienen más datos pero han anunciado esa posible investigación en definitiva queremos sin presuponer nada que se investigue si los mismos que nos robaron en caja madrid nos han robado también aquí creo que los ciudadanos tienen derecho

el partido popular ha venido denunciando el supuesto fraude en las ayudas sociales el partido socialista de euskadi insiste permanentemente

e incluso ha propuesto un incremento de las inspecciones fiscales no sería entendible que con los datos que tenemos no se lleve a cabo esta investigación que nosotros

a sí mismos o pretendan defender determinados intereses de partido o los intereses de determinadas personas por tanto esto es lo que proponemos

una investigación una inspección profunda para

en el pasado las retribuciones y los gastos de representación de sus consejeros así como la tributación de cada uno de ellos durante todo este tiempo todo ello ya digo con el objetivo de despejar cualquier duda en relación al cumplimiento escrupuloso de la legalidad por parte de las entidades financieras y de quienes las dirigieron propuesta y espero que pueda ser aprobada no sé si por todos pero al menos por una mayoría de grupos parlamentarios de esta cámara los ciudadanos están hartos exigen medidas claras y contundentes y desde luego esta sería una de las medidas que nosotros consideramos absolutamente razonable nada más y gracias